a decir verdad nuestro grupo parlamentario lleva prácticamente veinticuatro horas

recabar el apoyo del partido socialista para esta iniciativa porque presentamos una proposición no de ley que lo que pretendía

dijese claramente que los presupuestos generales del estado son malos para euskadi y para el conjunto de la sociedad

debería estar de acuerdo con esto pero parece ser que les ha pesado más sus pactos de gobierno con el partido nacionalista vasco que posicionarse claramente en la cámara con un grupo como el nuestro

transaccionar con nosotros la iniciativa a pesar de que hemos hecho

auténticos esfuerzos para poder llegar a un acuerdo pero ustedes preferían otra foto o al parecer les daba miedo estropear

nosotros solamente pretendíamos hoy con esta iniciativa que esta cámara dijese claramente lo que entendemos que opina

del estado que estos presupuestos generales son los presupuestos generales del partido popular los presupuestos de los recortes de la derecha neoliberal los presupuestos generales para el dos mil diecisiete presentados por el gobierno del partido popular

una drástica reducción del déficit público sobre el resto de objetivos de política económica entre ellos la creación de empleo y la calidad del mismo españa

ha sido durante los últimos años la campeona del ajuste fiscal y presupuestario de la unión europea la campeona de los recortes lo que ayuda a entender entre otras cosas

el gobierno del partido popular se ha centrado en reducir el déficit público a base de recortar

y de devaluar las condiciones laborales con estos presupuestos generales el gobierno del estado se reafirma en esta prioridad política y quien ahora respaldan los mismos el partido nacionalista vasco colabora con su apoyo

gracias a estas políticas españa es uno de los países europeos donde más han aumentado las desigualdades desde el inicio de la crisis

entre los niveles más elevados de inequidad de pobreza y de exclusión social en el marco de la unión europea el índice de desigualdad se ha mantenido estable en países de la euro zona en un valor en torno al treinta en españa en cambio del treinta y uno al treinta y cinco en los últimos años uno de los valores más elevados de nuestro entorno españa es uno de los países de la unión europea donde la desigualdad entre el veinte por ciento más rico y el veinte por ciento más pobre es una de las más elevadas y no deja de crecer hoy tener un trabajo en españa

puesto que casi el quince por ciento de los trabajadores y trabajadoras está en dicha situación como consecuencia

la erosión de ese llamado estado de bienestar por las políticas de recortes en los consecutivos presupuestos generales del estado explica esta situación españa de acuerdo con los datos más recientes del eurostat mantiene un déficit estructural

desigualdades erradicar la pobreza y la exclusión social estos presupuestos generales del estado se empeñan en reducir el déficit público a costa de aumentar el déficit social

a los que ya nos tiene acostumbrados el partido popular la novedad con los años anteriores será el apoyo del partido nacionalista vasco a los mismos algo que negaba el principal partido del gobierno vasco hasta hace cuatro días acusándonos a quienes decíamos que estos acabaría siendo así casi casi de ver fantasmas pues bien

no solo ha acabado entendiéndose con el partido popular como veníamos diciendo sino que ha acabado siendo la bombona de oxígeno que tanto necesitaba el ejecutivo de mariano rajoy

y asolado por la corrupción brutal de su partido no hubiera podido resistir mucho más los presupuestos generales del estado presentados para dos mil diecisiete

al contrario son los presupuestos de la consolidación de todos los recortes producidos desde la llegada del partido popular al gobierno los presupuestos generales del estado dos mil diecisiete incluyen recortes importantes

en todas las materias la única política de gasto que se incrementa de manera significativa en ellos ha sido defensa que lleva ya

además hay una ausencia total de planes para impulsar la sostenibilidad y la rápida reducción de las emisiones contaminantes el programa de prevención de la contaminación y actuación contra el cambio climático es uno de los que mayores recortes ha sufrido lo más preocupante es que estos recortes se hacen en servicios públicos fundamentales es decir al final en sanidad en vivienda y en otras muchas cuestiones y nos afectan también a euskadi en términos de ingresos los presupuestos generales del partido popular son el resultado de unas de las peores políticas en materia tributaria que ha vivido españa

además de mermar la capacidad recaudatoria del estado y por ende la capacidad de financiar servicios públicos fundamentales la política tributaria del partido popular

progresiva la participación de los ingresos tributarios se ha modificado de manera regresiva incrementando la participación de los impuestos indirectos y reduciendo la de los directos

y se ha mantenido la imposición sobre el trabajo cada vez pagan más los trabajadores

el capital algo que pasa en euskadi y algo que pasa en el conjunto del estado así se han reducido las rentas del trabajo

las consecuencias de todas estas decisiones sobre las condiciones de vida de la mayor parte de la población en el conjunto del estado son dramáticas y apoyar esos presupuestos es apoyar esas decisiones no solo quien propone esos presupuestos

está siendo cómplice de las consecuencias de esas políticas del partido popular la política de austeridad extrema ha causado que en dos mil diecisiete

al de hace una década mientras que durante la crisis países como alemania o francia tuvieron una productividad que cayó sí porque caía la producción pero se mantenía el trabajo en españa

la tasa de temporalidad en enero de dos mil doce era de diecinueve por ciento y en el último trimestre de dos mil dieciséis era del veintidós por ciento y en aumento

estos presupuestos van a traer por lo tanto más explotación y más precariedad sin resolver además el problema grave de desempleo

además es irresponsable la bajada de inversión pública que recogen los presupuestos y en particular el impacto territorial de la misma

se han reducido cerca del tres por ciento algunas bajadas a nivel autonómico llegan al treinta por ciento como el caso de navarra o el ochenta por ciento como en el caso de asturias

de estas cuestiones los presupuestos generales del estado sobre todo perpetuán la brecha social generada por las políticas de austeridad fiscal y devaluación salarial y evita generar nuevos paradigmas de crecimiento más inclusivo

y más verde los presupuestos generales impiden trasladar las posibles ventajas del crecimiento a la mayoría social aseguran por el contrario que estas se queden en manos de unos pocos

y abordar los ingresos aumentando la inflación eso sí sin compensar de sus efectos a los colectivos más vulnerables pensionistas también los de euskadi

dependientes también los de euskadi estudiantes becados etcétera y desde luego también a los empleados públicos que verán cómo sus salarios pierden nuevamente poder adquisitivo

y una tasa de desempleo de larga duración de más de cincuenta y siete por ciento el gobierno recorta el gasto en políticas de empleo debilita el papel de los servicios públicos de empleo y olvida la necesidad de mejorar la empleabilidad e inserción de las personas en desempleo

y el partido nacionalista vasco va a ser cómplice de esto también millónes de personas que tienen que ver sin embargo cada día en sus televisores

que se produce por parte de corruptores y corruptos quienes diseñan estos presupuestos generales del estado pertenecen a un partido carcomido por la corrupción de manera

son cómplices cuando menos de mantener en el poder a ese partido de manera especial

que el partido popular a pesar de no contar con mayoría en el congreso de los diputados mantiene sus políticas recentralizadoras y su concepción de españa negadora de una realidad plurinacional también alguien puede ser cómplice pensamos que no es el momento de apuntalar al partido popular en madrid sino de aprovechar su debilidad parlamentaria para propiciar cambios también en un modelo de estado el surgido de la transición que se demuestra agotado o inútil

y de los pueblos debemos rechazar desde este parlamento unos presupuestos al servicio de las élites unos presupuestos

contra los pensionistas contra las personas en desempleo unos presupuestos que están construidos para lograr el objetivo de déficit metiendo la tijera al gasto social nuevamente metiendo la tijera a los salarios a los empleos públicos a las pensiones

y de los servicios sociales solicitemos desde esta cámara el rechazo de los presupuestos generales del estado a las fuerzas de la oposición en el congreso pues cuenta con mayoría suficiente para tumbarlos y empezar a revertir las políticas del partido popular el pacto por el cual el partido nacionalista vasco

es infumable porque supone avalar la corrupción supone avalar los recortes y supone también avalar la posición del partido popular en cataluña

una de las palabras más utilizadas para bendecir este pacto ha sido la de estabilidad la han utilizado desde el lehendakari

o montoro y les voy a dar la razón es verdad este acuerdo da estabilidad

a la corrupción del partido popular da estabilidad a la reforma laboral que ha destruido miles de empleos de calidad en euskadi

por exclusión de las mujeres del mundo laboral y por el fin de la negociación colectiva todo el poder para la patronal da estabilidad al recorte de las pensiones que solo en lo que vamos de año ha provocado una pérdida de poder adquisitivo de las mismas de un tres por ciento

a la falta de reposición del funcionariado imprescindible para un buen funcionamiento de los servicios públicos como educación

y da estabilidad al recorte de la financiación de la ley de dependencia imprescindible para que las personas en euskadi puedan tener una atención de calidad en situaciones de dependencia y que esos cuidados no sigan recayendo en las mujeres como siempre

una ley que supone una vuelta a un sistema segregador y elitista en la educación da estabilidad

con el propósito de cerrar la boca a quien protesta entre ellos

esta es la estabilidad que el partido nacionalista vasco está dando al partido popular estabilidad que tiene consecuencias en euskadi por mucho que el pnv pretenda vender las bondades del acuerdo el pnv se queja muchas veces de las imposiciones de madrid y bruselas pero luego se erige en el mejor sostén de los responsables

nosotros entendíamos que el partido nacionalista vasco no iba a respaldar esta propuesta pero entendíamos que se podía llegar a un acuerdo con el partido socialista de euskadi porque dicen que están en contra de estos presupuestos generales

les hemos ofrecido un acuerdo un buen acuerdo un buen entendimiento les hemos ofrecido prácticamente firmar su enmienda

a hacer un ejercicio didáctico quien quiera le entrego luego la propuesta de enmienda transaccional que yo he entregado al partido socialista es prácticamente prácticamente igual que la enmienda que ellos nos planteaban en aras de llegar

para que se pudiera visualizar en esta cámara y ese era nuestro único objetivo algo que creemos que corresponde con la opinión mayoritaria de la ciudadanía vasca y es que esta cámara el parlamento vasco dijese que los presupuestos generales del estado

partido socialista no ha querido le ha pesado más la presión del partido nacionalista vasco ustedes verán nosotros desde luego somos responsables y hemos venido a votar lo que queríamos que saliese de esta cámara
amaitzen joan lo proponga quien lo proponga y se proponga como se proponga es decir que los presupuestos generales del estado del partido popular son

gracias presidenta lehendakari consejero buenos días a todos

que propone por un lado que el parlamento vasco rechace el proyecto de presupuestos generales del estado porque estos presupuestos consolidan la desigualdad acentuada durante los años de crisis

aquellas reformas que han provocado un empobrecimiento de gran parte de la población

además impulsan medidas que no garantizan la calidad en el empleo ni el blindaje de los servicios públicos ni los derechos sociales y renuncian a un nuevo modelo económico y la enmienda socialista pretende también que el parlamento vasco al gobierno de españa a proponer a la mayor brevedad un nuevo sistema de financiación autonómica que respetando las singularidades reconocidas a euskadi

la financiación de todos los servicios públicos de su competencia de forma que se garantice la igualdad y la solidaridad para el conjunto de los españoles y españolas

el debate de hoy es una oportunidad para explicar tal y como venimos defendiendo históricamente los socialistas la idea de una españa en la que no entendemos el progreso de euskadi sin compartirlo con el progreso de asturianos de andaluces de catalanes o de gallegos

pero con un objetivo compartido de un proyecto común por eso rechazamos los presupuestos generales del estado porque creemos que estos presupuestos perjudican a ese proyecto común y defendemos un sistema solidario que avale la forma en la que hemos decidido organizar

del estado esa es la idea que los socialistas proponemos en este debate y hemos planteado la enmienda como alternativa a la propuesta de bildu y podemos por coherencia

registró una enmienda de totalidad al proyecto de ley de presupuestos generales del estado para dos mil diecisiete solicitó la devolución de esos presupuestos

y segundo porque lamento decirlo además no nos llegamos a creer que las intervenciones de las iniciativas presentadas por bildu y podemos busquen realmente

hablando de soberanía y de independencia y podemos porque ante esa oferta de negociación lo primero que hizo fue contarlo a la prensa y luego nos llamó y esa no es la manera de tejer complicidades con el partido socialista de euskadi y no vamos a despreciar tampoco esa muestra ahora de preocupación de la izquierda abertzale hacia los trabajadores y trabajadoras

mejor eso que cuando nos traen iniciativas que abogan por abandonar ese proyecto común aunque visto lo visto y oído lo oído en la anterior interpelación que realizó

y cómo ha acabado hoy su intervención pues en fin las cosas no van por el camino que hubiesemos deseado los socialistas y más bien parece como dijo

hace un par de semanas que bildu pretende reproducir aquí el debate en el congreso porque allí no consiguen suficiente eco y de paso ahondan en esa guerra particular que mantienen

que se complementa con escraches pancartas y otro tipo de actuaciones lamentables y en cuanto a la iniciativa de elkarrekin podemos también cae en ese error replicante porque a pesar de que en la parte dispositiva habla de los perjuicios a la comunidad autónoma vasca en la justificación

no ofrece una sola razón de cuáles son los perjuicios yo no digo que no los haya cuidado que no las justifica y que por tanto esta iniciativa da toda la impresión de corresponderse a ese listado de propuestas plantillas que se llevan a todas partes que los grupos políticos llevan a cualquier lugar donde hay que presentar alguna propuesta por el estilo pero bueno

nuestro rechazo a unas cuentas que perjudican al conjunto de españoles y españolas también a los vascos sí porque no se deroga la reforma laboral ni el medicamentazo ni se incrementan las pensiones de forma suficiente por citar tres cuestiones que nosotros en euskadi con nuestra propia capacidad de autogobierno con nuestras propias competencias podemos compensar y paliar y también nos perjudica a los vascos porque perjudica a asturianos

y nos sentimos concernidos por ello y la razón fundamental de nuestro rechazo

en tramitación es que el crecimiento económico que auguran no se traduce luego en mejoras para la gente

que el crecimiento económico tiene que ser el motor de la recuperación de la cohesión social si hay algo en lo que creemos radicalmente es que los mejores momentos

de la historia de españa y también de la historia de euskadi los de mayor progreso social se han producido cuando se ha impulsado el crecimiento económico y a la vez ha habido

y eso no está plasmado en estas cuentas del estado para el dos mil diecisiete el pib aumentado o augurado por los presupuesto generales del estado

ni va a llegar al bolsillo de los hogares de miles de conciudadanos y conciudadanas y mientras eso pasa y el gobierno de rajoy habla de borracheras de gasto público su proyecto renuncia deliberadamente a una reforma fiscal justa que mejore la obtención de recursos

mientras el gobierno de rajoy presume de datos de empleo los trabajadores y trabajadoras siguen desprotegidos y forzados a ocupaciones temporales

ni salarios dignos para atender a sus necesidades más básicas ni cotizaciones para disfrutar luego de pensiones futuras mientras el gobierno de rajoy celebra el presente los jóvenes del conjunto de españa siguen sin encontrar

mientras el gobierno de rajoy favorece que aumenten las rentas más altas las tasas de pobreza infantil aumentan en el país y eso ya no es un empecinamiento del discurso socialista sino que es un análisis compartido por un organismo

que en un reciente informe dice que la crisis ha dejado en españa cicatrices que menoscaban el bienestar siendo las más visibles unos niveles todavía muy elevados de desempleo pobreza y desigualdad la falta de empleo de calidad y el alto número de trabajadores temporales

impiden que alcancen suficientes horas de trabajo remunerado y unos ingresos adecuados los socialistas vascos defendemos para euskadi y para toda españa

quienes más la han sufrido defendemos recuperar la economía pero sobre todo que se recuperen los ciudadanos y ciudadanas y eso no va a ocurrir con unos presupuestos como estos donde todo el peso de la reducción del déficit siga cayendo sobre las espaldas del gasto público sin que se modifiquen para nada los ingresos unas cuentas que son resignadas

que renuncian a una apuesta mínima por el cambio de ciclo económico aquel que pueda apostar por la modernización y que requiere el tejido productivo

por ejemplo hace dos semanas la enmienda

de los presupuestos no prosperó y de ahí que se hayan presentado

intentando conformar una alternativa de política económica a la del gobierno de rajoy

están siendo vetadas en la comisión para su tratamiento como decía unas enmiendas que lo que tienen como objetivo es el lograr un crecimiento económico inclusivo desplegando para ello un conjunto de acciones que por una parte recuperen y consoliden las políticas de igualdad y del estado de bienestar y por otra renuevan

de la productividad de la economía española los socialistas partimos de una reforma tributaria para que pague el que pudiendo y debiendo no paga

de cohesión y de protección social de educación en sanidad en empleo de calidad en innovación y todo esto que acabo de decir seguro que les suena al menos a los que estuvieron la pasada legislatura en esta cámara y fueron parlamentarios y parlamentarias porque estos argumentos que exponemos hoy para explicar nuestra radical oposición

son exactamente los mismos argumentos que expusimos y utilizamos en su día para oponernos a los primeros presupuestos del gobierno vasco en el pasado mandato

desde el ejecutivo y los hemos incorporado con compromisos de gobierno en el ejecutivo actual en euskadi lo hemos podido hacer a pesar de cohabitar con las políticas restrictivas de rajoy porque hemos demostrado voluntad política y capacidad de acuerdo para poder contar con esos recursos adicionales

reforma fiscal incluyendo las partidas concretas que compensan a quienes padecen el medicamentazo o la pobreza energética si los vascos y vascas podemos hacer esto hoy es porque hemos hecho valer nuestras capacidades y lo hacemos con la capacidad que nos ofrece el concierto económico y lo hacemos con todas las capacidades que nos ofrece también el estatuto de gernika la defensa incuestionable por nuestra parte

no impide que los socialistas vascos reclamemos hoy un sistema justo para el conjunto de españoles y españolas ese sistema justo de financiación autonómica tiene que ver con estos presupuestos ahora a debate que plantean recortes y reformas temerarias que ponen en peligro el estado de bienestar e impiden que el sistema de financiación autonómico actual permita a todas las autonomías de españa garantizar los servicios que prestan la singularidad no puede

con la solidaridad al contrario defendemos nuestra singularidad y la solidaridad

de los agravios y por eso rechazamos el proyecto presupuestario del gobierno de rajoy esto es lo que los socialistas defendemos en nuestra enmienda a la que invitamos a sumarse a quienes en esta cámara defiendan un proyecto solidario con el resto de pueblos
y trabajadores y trabajadoras de españa nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea zuzenketak aurkeztu

porque creo que llevamos ya dos o tres al menos sobre lo mismo desde que aprobamos los presupuestos del gobierno vasco oyendo los mismos argumentos

hoy tenemos una moción de bildu una pnl de podemos y una enmienda del partido socialista la moción de bildu es para meterle el dedo en el ojo al pnv por pactar con el partido popular igual que en los presupuestos del estado

al partido socialista porque está en el gobierno vasco y a ver qué van a decir

y la del partido socialista pues pican como panchitos y

yo no sé aquí la coherencia de algunos parlamentarios o partidos políticos pero cuando dicen que no se revierten

incluidos los vascos fue la congelación de pensiones del partido socialista

un cinco por ciento del partido socialista o mandar al paro a más del veinticinco por ciento de la población gracias al partido

sí que revierten porque las pensiones suben los funcionarios suben sus sueldos y el paro está en menos del dieciocho por ciento yo siento que a algunos les molesten estos datos y estas cifras porque les gustaría que fueran peor pero no es así entonces las cosas sí van revertiendo hombre también me sorprende

es que en vez de aprobarse un presupuesto que parece que al menos van a respaldar cinco partidos políticos distintos prefieran la prórroga de un presupuesto que solo lo aprobó el partido popular porque al parecer les parece mejor porque eso es lo que están planteando

se prorroguen los del año dos mil dieciséis que es lo que está ocurriendo ahora en estos momentos prefieren los presupuestos del dos mil dieciséis que aprobó el partido popular en solitario porque ese es el planteamiento que nos están haciendo aquí hombre y al partido socialista que nos hace una enmienda

autonómica que respete la singularidad de euskadi y navarra

se respeta que garantice al conjunto de las comunidades autónomas la financiación de los servicios públicos de su competencia

solo les voy a recordar que la actual ley de financiación es la que aprobaron

con los nacionalistas catalanes entre otros supongo que si están pidiendo esto es porque ustedes reconocen que esa ley que ustedes

ni la solidaridad del resto de los españoles porque lo demás no sé cómo entender su propuesta es que está vigente su ley de financiación autonómica

están pidiendo que la modifiquemos corriendo para garantizar estas cosas

que modifiquemos su ley tan buena tan solidaria tan equitativa a la hora de repartir los ingresos entre todas las comunidades autónomas yo por eso le digo que en fin un poco de coherencia

y cuando se hablan de los presupuestos del estado y además se aprueba el techo de gasto

que le recuerdo que es lo que hicieron no hacen tanto tiempo para luego plantear que hay que gastar más dinero del que ustedes han acordado en el techo de gasto

si ustedes fijan el techo de gasto y quieren hacer enmiendas pues tendrán que decir quitamos de aquí y ponemos aquí cosa que no han hecho

y así seguimos cobrando y garantizando que los pensionistas vascos van a seguir cobrando las pensiones

en nada pero en nada y en fiscalidad de qué vamos a hablar

vamos a ver aquí cuando todos hablan de la descentralización de las competencias yo

cuando usted nos habla señor hernández de se

cómo se creen que funciona esto qué recortes hay

se hacen recortes si también lo dijeron en los presupuestos del gobierno vasco

es que en los dos casos o sea el mayor gasto social de la historia está en estos presupuestos qué quiere que le diga

casualmente este año se va a batir el récord de recaudación en españa y en el país vasco sí sí de recaudación fiscal no no desde ahora

de qué están hablando o cuando el psoe nos habla de la reforma fiscal en españa que cuando llegamos las grandes empresas pagaban

cero en madrid y aquí porque se rigen por la normativa de madrid

nos está hablando el partido socialista en españa que mejore la recaudación

ya está mejorando y está mejorando y mucho con las reformas que se han hecho para que esas grandes empresas paguen que antes no pagaban

también obtiene cifras de récord de recaudación no de estimación sino de recaudación

pero de qué servicios sociales nos habla de los que dependen del gobierno vasco de los que es competencia el gobierno vasco

qué discurso están haciendo aquí están haciendo todos el discurso del paripé el que llevamos repitiendo desde los presupuestos del gobierno vasco sin presentar ninguna alternativa que nos diga que es que la ley de presupuestos no

no puede y eso además ya lo sabe usted y además no es conveniente porque ha dado sus frutos esa reforma laboral que es la que hicieron los alemanes hace más de diez años

sí y los franceses y cuando nos hablan de recorte de pensiones

en europa el récord de bajada de las pensiones lo tiene grecia que creo que gobiernan sus homónimos y sus homónimos más del treinta por ciento les han bajado las pensiones a los griegos y el segundo país

que en fin no gobernaba la derecha extrema que ustedes plantean

yo no me voy a extender mucho más porque aquí estamos repitiendo yo veo

pactó los presupuestos del gobierno vasco y pactamos nosotros lo sentimos mucho no sabíamos que iban a llevar a esa situación tan preocupante

le sigue molestando que el gobierno de españa y el partido popular

muchos más votos y esperemos que los consigamos y que se puedan aprobar porque sí será bueno para españa y será bueno para el país vasco

los de podemos cuando se exagera tanto la crítica

yo creo que queda en ridículo el que las hace hoy trabajan muchas más mujeres que antes

gracias a dios y a la reforma laboral y trabajan muchos más jóvenes

y sabe qué si mantenemos un poco la estabilidad ustedes siguen haciendo la demagogia pero no consiguen estropear las cosas pues podremos seguir adelante

encuentre empleo que nuestros jóvenes no tengan que irse a buscarlo fuera y por si se me había olvidado decirlo vamos a votar en contra porque sí somos partidarios de los presupuestos del estado

un mínimo de valentía política no se escuden ustedes en los presupuestos generales del estado un ejercicio de escapismo político de falta de valentía no voy a calificar de cobardía pero falta de valentía traigan ustedes aquí el acuerdo propongan su rechazo

de los presupuestos generales del estado que tiene muchos y múltiples claro y la segunda cuestión que ha estado en el contexto

akordio bat egiteko bueno al partido popular

lo han elegido los españoles el pnv no votó la investidura de esta cámara después de haber votado los vascos ha salido

ese es el lehendakari vasco uno ha sido elegido por los españoles y otro elegido por los vascos a partir de ahí el partido nacionalista vasco

una agenda política para negociar con el gobierno español

de inquilino con el que resulte en la moncloa entonces

ha negociado con el partido nacionalista vasco porque sentía necesidad yo diría que extrema necesidad porque cuando ha tenido

nos ha ninguneado absolutamente que no es de recibo que determinados acuerdos que tenía que tener su recorrido institucional tasado y legal

que haber tenido acuerdo fruto en tiempo pasado y que eso no se ha producido también ha sido por esa mayoría absoluta

no solamente los gobiernos del partido popular también ha habido gobiernos socialistas con mayoría absoluta con respecto a las instituciones vascas eso que

eso es la política también en el día a día porque hay

en españa que la transición se cedió en exceso

los poderes transferidos indebidamente según algunos pero claro cuando entramos a un debate como es el debate presupuestario uno tiene que saber exactamente dónde están los límites de un debate presupuestario en su caso dónde se ubican las potencialidades de un entendimiento o de un acuerdo pero

vayamos a ese contexto tenemos un proyecto de presupuesto

aquí en ocasiones anteriores se nos ha dicho que bueno hemos intentado vestir revestir que si el cupo

un empate que yo mismo había intentado introducir en el debate otras cuestiones

alonso raudo y veloz a desmentir con el consiguiente alivio para la señora

porque por no tener no tiene ni un plan para sus presos pero vamos a contar también la verdad sobre esa materia

y que seremos responsables de esas consecuencias indeseables

muchos capítulos entre otros las dos liquidaciones de los dos quinquenios establecimiento del año base etcétera

posicionamiento político diciendo ustedes los de podemos y también los de bildu que van a votar a favor del acuerdo

en el cupo sería la de unirse a la negociación de la comunidad autónoma los intereses y textos son comunes las diferencias anecdóticas cuando el cuatro de mayo conjuntamente ustedes encomienda emplazan al gobierno a que explique

si se ha conseguido el acuerdo dónde está el problema dónde está el problema por qué no traen ustedes una proposición no de ley

para que se rechacen los acuerdos desde esta cámara por qué no tiene esa mínima valentía porque no tienen nada que decir

que me quieren decir ustedes elkarrekin podemos más allá de las enmiendas universalistas generalistas que nos afectan a todos a la clase trabajadora

me quieren decir ustedes señores de bildu más allá de la enmienda de totalidad que han presentado los presupuestos generales del estado

oskar matute le metía un toque internacionalista al grupo pero

que fíjense ustedes si hay transición de esquema vasco a esquema español la enmienda me quieren decir ustedes qué enmiendas han presentado relacionadas directamente con intereses y problemática vasca

por si cupiera algún margen de negociación con el partido popular

cuántas enmiendas han presentado más allá de la reducción de cupo

de defensa corona etcétera etcétera para sufragar

o presupuestar otra serie de materias me quieren decir qué enmiendas y por qué

usted estando en la diputación de gipuzkoa por qué pide no pagar la parte

también a la corona y al ejército qué enmiendas han presentado en madrid vienen aquí con una enmienda con la moción genérica de desaprobación

porque aquí esto de que rajoy está inhabilitado para

cuando le afecta al otro porque cuando le afecta a uno me quieren decir ustedes cuando se llega a un acuerdo con el fiscal de la audiencia nacional del reino de españa

dirigentes de la izquierda abertzale por qué se llega a un acuerdo por qué ah eso es válido

y es rechazable cuando lo hace el otro habrá que razonar cuando menos porque el señor rajoy

corrupto no estaba impoluto antes y tampoco hace mes y medio cuando el lehendakari le visita se reúnen

de eta es el mismo rajoy es el mismo rajoy no es otro y hablando del tema por cierto

cinco minutos antes de la interpelación de la señora larraitz arzuaga pregunta al lehendakari sobre política penitenciaria

está en la agenda política evidentemente no se ha vinculado con la materia presupuestaria pero está en la agenda pero sabe lo grave del tema en su intervención pasada

lo que le corroe es que el pnv tenga un plan tenga un plan y le alivia el

alfonso alonso y lo grabe del tema es que ustedes
por no tener no tiene ni un plan amaitzen joan egibar jauna oraintxe eta

egoki deritzot orain con los panchitos por cierto un comentario de muy mal gusto simplemente decirle que no ofende quien quiere sino quien puede y usted no puede ofender a eh bildu eh bidu tiene clarísimo cuál es el planteamiento que tiene con respecto al partido popular

y con respecto al gobierno de españa en general y con lo que nos viene de españa en general que es gracias a dios y a la reforma laboral no malo sino horroroso

en el sentido de que nuestro grupo parlamentario nuestra coalición se llama elkarrekin podemos no solo podemos quizás a ustedes les parezca una tontería pero para nosotros es un valor porque

de tres grupos y a nosotros nos gusta dirigirnos a los demás con el nombre que ellos han decidido

yo estoy encantado en que me lo recuerden el objetivo que nosotros teníamos lo he explicado

antes y era que esta cámara se posicionase claramente contra los presupuestos generales del estado no era tanto

o como consecuencia de él esos presupuestos generales se vayan a aprobar sino que esta cámara voluntad de los votos en euskadi reflejase lo que nosotros entendemos que hoy en día es voluntad de la ciudadanía de euskadi y es decir que los presupuestos generales del estado que presenta el partido popular son malos

y son malos para el conjunto de la ciudadanía del estado ese era nuestro objetivo

nosotros hemos intentado que el partido socialista firmase con nosotros esa iniciativa y no valen excusas nosotros

una enmienda de transacción que como he dicho antes era prácticamente igual que lo que ellos

como todos los miércoles ayer salimos a explicarles las iniciativas que nosotros traíamos a esta cámara y sí yo en esa rueda de prensa emplacé al partido socialista

ustedes están en contra de los presupuestos generales del estado no por tanto es lógico

que se vayan a rechazar esos presupuestos generales que yo les emplace

entonces se está usted poniendo unas excusas un tanto cutres

la foto que tienen ustedes con el partido nacionalista vasco no es nuestro problema nosotros vamos a ser responsables y como he dicho antes nuestro objetivo y lo va a demostrar la votación

la voluntad de decir que el parlamento vasco rechaza los presupuestos generales del partido popular en madrid

porque son unos presupuestos que son malos sí para la ciudadanía de todo el estado y eso a nosotros nos preocupa nos preocupa muchísimo y son malos además para la ciudadanía de euskadi más allá de que tengamos una altísima capacidad de competencias efectivamente pero nos afectan y nos afectan mucho o no nos afectan las prestaciones por desempleo o no nos afectan las pensiones claro que nos afectan pero además nos preocupa cómo afectan al conjunto del estado

mucho cómo afecta al conjunto del estado yo no sé si soy demagogo o no creo que no pero lo que no soy es un mentiroso y yo no he dicho que las mujeres no trabajen

excluyen a las mujeres del mercado laboral y esos son datos objetivos que están ahí consúltelos señor damborenea porque lo que ha pasado en estos años con las mujeres en el mundo laboral está demostrable objetivamente nosotros no es que hayamos sido ni valientes

que nos parece importante que esta cámara diga porque creemos que es voluntad mayoritaria en euskadi donde por cierto en las elecciones generales fue nuestra coalición la que ganó las elecciones

y nuestro objetivo era ese no era hablar tanto del acuerdo nuestro objetivo es que esta cámara y creo

es que diga que esos presupuestos generales son malos para la ciudadanía ese era nuestro objetivo nosotros no le vamos a negar la legitimidad

por mí negocien ustedes y acuerden con el partido popular no tengo ningún problema

nosotros criticamos los contenidos y estamos criticando los presupuestos generales que ustedes van a votar en madrid eso es lo que estamos criticando y eso es lo que queremos

y diga que no son unos presupuestos buenos para el conjunto de la ciudadanía

nuestro objetivo si se vota por puntos la enmienda del partido socialista es posible que ese objetivo se consiga nosotros ya dijimos que vamos a ser también una oposición responsable si nos parece que eso es lo que tiene que hacer esta cámara nos da igual

nuestros objetivos se habrán cumplido y el parlamento de las vascas y los vascos habrá dicho hoy que los presupuestos generales del estado del partido popular son malos

sí gracias presidenta a los socialistas vascos

una buena oportunidad la de hoy para debatir aquí en el parlamento sobre la defensa de nuestra singularidad haciéndola

con el resto de las comunidades autónomas españolas y también nos parece interesante debatir sobre el rechazo a unos presupuestos que seguimos pensando señor damborenea que son claudicantes que contienen previsiones de ingresos irreales no lo décimos nosotros lo dice la autoridad fiscal

presupuestos que no contribuyen a una recuperación inclusiva y que no apuestan por la modernización de la economía española y que perjudican además a la mayoría de la ciudadanía española hoy seguramente no nos encontraríamos aquí en este debate si hace

otra actitud se hubiera dado por parte de los partidos políticos que impidieron con su voto en el congreso de los diputados un programa alternativo un programa que rechazaron y además en el que estaba prevista una reforma fiscal que se aproximaba mucho a la que teníamos logramos los socialistas implantar también aquí en euskadi

reforzado en hogares con menores o el incremento incluso de la inversión

de la reforma laboral entonces se rechazó todo eso que

y porque entendemos que es lo justo los socialistas hemos vuelto a plantearlo en las casi dos mil enmiendas que hemos previsto debatir y discutir

hace dos días se empezó a implantar un veto para las enmiendas parciales en el congreso de los diputados y los socialistas vascos nos oponemos a unas cuentas que consolidan esa reforma laboral o los recortes sanitarios y defendemos todos los acuerdo entre instituciones que permitan desarrollar lo que

nos hemos comprometido a hacer aquí en euskadi y uno de esos compromisos era el acuerdo sobre el cupo esperamos que sea una herramienta más de tranquilidad para con nuestras competencias con las del autogobierno podamos frenar los desmanes de las políticas del partido popular que han ocasionado además en materia laboral o contra el estado del bienestar

perjuicios el estado de bienestar el partido popular lo pretende dejar morir o al menos privatizarlo en muchos de sus casos y en euskadi el partido nacionalista vasco para aquellos que crean que nos sentimos incómodos y no para nada

en el gobierno vasco y atendiendo a nuestras tareas y a la responsabilidad de gobierno y como decía en euskadi el partido nacionalista vasco se ha comprometido con los socialistas vascos

a las que el partido popular está aplicando o pretende aplicar en españa nosotros los socialistas sí tenemos una idea global de españa y lo que nos parece malo para la ciudadanía vasca

para la ciudadanía vasca tampoco lo queremos para el resto de la ciudadanía española sea cual sea la autonomía a la que pertenezca esa ciudadanía

a un acuerdo con las autonomías sobre su financiación porque se hace más necesario que nunca un nuevo sistema de financiación autonómica que sea justo y equitativo y que dé certeza estabilidad y equilibrio al sistema del reparto de los recursos públicos señor damborenea

pero también se revisó en el dos mil trece en varios meses también se revisó en el dos mil catorce

y todos somos aquí muy conscientes de cuál es el problema que tienen las autonomías en españa para poder

sus temas competenciales en materia de servicios públicos y no es la misma situación

que tienen otras autonomías por eso defendemos que desde la singularidad

se aplique el cuento el señor rajoy se ponga a trabajar para solventar ese problema y acabo volviendo un poco al inicio de lo que era mi intervención es que

no tenía o no quería plantear la propuesta de rechazo a los presupuestos era otra era el manifestar cómo siendo independientes podíamos ser mejores y en eso no íbamos a estar de acuerdo otro de los temas del elkarrekin podemos quizás ustedes tengan este sistema

que plantean contra el señor rajoy pero desde luego eso no es la metodología de trabajo de los socialistas vascos si se hubiera querido de verdad un acuerdo

por lo tanto permítame que desconfíe de su voluntad de pactar no obstante los socialistas queremos que si algo puede ser factible y sacar adelante en este debate estamos dispuestos a que nuestra enmienda

los socialistas vascos vamos a votar nuestra enmienda a los dos puntos a favor porque entendemos que plantea el rechazo a los presupuestos de rajoy y porque plantea la defensa de un sistema de financiación autonómica que debe ser nuevo y además mantener la solidaridad entre todos los pueblos de españa y que respete y avale la singularidades de euskadi y navarra

los vascos le hemos votado lehendakari y los vascos también le hemos votado

los dos les hemos votado los vascos cada vasco

yo creo que queda claro que el debate no es sobre los presupuestos del estado

yo creo que ha quedado claro que bildu ha venido a sacudir al pnv por cierto yo a ustedes no les he llamado panchitos

no se adjudiquen lo que no he dicho y por si no lo sabe es el alevín del besugo

panchito se va convirtiendo en besugo y al final algunos

ustedes dicen que el pnv tiene un problema para explicar el acuerdo al que ha llegado yo no sé si el pnv tiene algún problema lo que yo no les veo a ninguno de ustedes es decir

pero es que ustedes quieren pactar con el gobierno del pp lo que pasa es que lo que ustedes quieren pactar con el gobierno del pp los del gobierno del pp no queremos pactarlo que es distinto y elkarrekin podemos que ha venido a sacudir al psoe les voy a decir solo una cosa mire usted

y son las que nos están sacando de la crisis y a partir de aquí haga usted la demagogia que quiera sobre el tema de las mujeres o sobre cualquier otro porque los datos

nos dice usted que estos presupuestos del estado prevén ingresos fiscales irreales

han aprobado el techo de gasto el techo de gasto es estos son los ingresos estos son los gastos

fiscales son irreales en lo que ustedes han aprobado claro un poco de coherencia que se lo he dicho al principio me habla de los recortes sanitarios

va a aplicar recortes sanitarios el señor consejero de este gobierno vasco de qué recorte nos está hablando la señora corcuera no están ustedes en este gobierno vasco

yo pensaba que habíamos ampliado que vamos a gastar más dinero más dinero en sanidad e incluso nosotros hemos presentado y se han aprobado enmiendas que incrementan el gasto

pero qué nos está viniendo a contar aquí dice el estado de bienestar el partido popular o lo privatiza o tal oiga el estado de bienestar social que ustedes lo dejaron quebrado

con la congelación de las pensiones incluida lo ha salvado el partido popular el gobierno del partido popular como siempre que llega al gobierno porque siempre llegamos para salvar el estado de bienestar social que ustedes los dejan quebrado

vuelven ustedes y lo vuelven a quebrar claro es cíclico en europa pasó durante muchos años verdad y aquí pues

a pedir el prestamo para pagar las pensiones y ahora igual

me dice el problema de las autonomías en españa es que ustedes tienen además un problema doble las autonomías en españa tienen un problema de financiación si no se aprueban los presupuestos del estado

quiénes son las comunidades autónomas qué gobiernos tienen más interés en que se aprueben las

porque como recauda el estado en su ley de presupuestos tiene que venir esa partida y está pero ustedes van a votar en contra de ese incremento en más de seis mil millónes de euros de financiación autonómica

no es verdad van a votar en contra van a votar en contra prefieren que se prorrogue la del año pasado y que aunque haya más ingresos fiscales no reciban nada

pero ese es su planteamiento de falta absoluta de coherencia y usted decía del año ochenta y dos

a la seguridad social hoy estamos en más de dieciocho millónes nos gustaría que todos cotizaran por la máxima pero vamos a ver si llegamos a los veinte

o tres años y a lo mejor aunque ustedes sigan diciendo que está todo muy mal y que nadie trabaja ni las mujeres ni nadie

la mayoría de los españoles pueda vivir mejor que es lo que está ocurriendo hoy que cuando nosotros llegamos al gobierno eskerrik asko

sentimos vergüenza corresponsables de las barbaridades

de euskal herria para avanzar como país han decidido una vez más buscar el acomodo en lo más rancio facha y corrupto de españa beno gu euskaldunak gara

o intranquilidad pero ni nos sentimos ni queremos ni necesitamos ser españoles

laguna izan daiteke el enemigo de mi enemigo es mi amigo

yo califiqué y sigo calificando de destrucción del adversario político que se ha practicado y se sigue practicando en esa

con el objetivo de continuar una serie de investigaciones cómo se justifica cuando por ejemplo

cuando se han producido todas esas periciales técnicas vienen ustedes

y piden auxilio a la unidad central operativa

con el auxilio técnico que precisen al objeto de que realicen una investigación que dictamine si los incrementos del presupuesto liquidado están justificados y se corresponden con trabajos realmente ejecutados para las obras gestionadas por la sociedad bidegi en la a pe uno eso se produce

después de todas las periciales auxilio auxilio

a la uco a la guardia civil amaitzen joan egibar jauna auxilio

como dice su hija y sus amigas buá chavala toma toma

más española desde luego no está muy arraigada en el soberanismo vasco buá chavala

el enemigo de mi enemigo es mi amigo

como vemos que el ejecutivo presidido por el señor urkullu tiene la

desproporcionada del euskera en las ofertas públicas de empleo en las ofertas públicas de empleo además que se han anunciado ya para esta legislatura a través de distintas convocatorias hemos considerado conveniente y dado que estamos al inicio de una nueva legislatura presentar

propuesta entendemos que con los anuncios y con la intención de seguir con la misma política lingüística este gobierno no tiene en cuenta una vez más la realidad sociolingüística de las distintas zonas el uso efectivo

ámbitos de la comunidad autónoma que no es el mismo que no se discrimine en el acceso

en la administración general de la comunidad autónoma del país vasco uste dugu horrexegatik komenigarria dela gai hau berriro honetara

berrikustea por ello hemos considerado como decía conveniente proponer otra vez esta iniciativa para debate en esta cámara que ya la hemos propuesto

de sucesivas legislaturas en algunas fue posible el acuerdo con el partido socialista socio de este gobierno

como mérito en relación a otros méritos y la pasada legislatura llegamos también a un acuerdo

en los que hoy hemos presentado esta iniciativa yo diría que de forma

planteamos que el gobierno vasco rectifique la política injusta y discriminatoria de exigir el conocimiento del euskera como requisito indispensable para optar a un empleo público y que se modifiquen los criterios de acceso a las ofertas públicas al objeto de que no se priorice el conocimiento del euskera sobre lo que es la capacitación técnica y la experiencia es decir modificar la normativa correspondiente a la asignación de perfiles lingüísticos de cada puesto que se adecue a la realidad sociolingüística

y también que se garantice y para ello se adopten cuantas medidas sean necesarias para garantizar el principio de acceso en condiciones de igualdad a la provisión de puestos de trabajo vemos que

el conocimiento del euskera debido a su exigencia y a su exigencia desproporcionada en relación a otros méritos o cómo se asignan los perfiles

el euskera no es un mérito más no se ha convertido en un plus más sino que es una auténtica traba a la hora de acceder a un puesto en la administración pública

que no se adecua a esa realidad sociolingüística a la que hacía referencia y por lo tanto esa mayor exigencia de perfiles

uso del euskera y desde luego con esa realidad sociolingüística y por otra parte la valoración del euskera su valoración excesiva

lleva también a que se produzcan claramente situaciones injustas y que todo ello produzca un malestar en los aspirantes y para muestra un botón en una de las últimas convocatorias para una convocatoria de cuatrocientos diecinueve plazas

personas de esas dieciséis mil nueve personas

acreditado pero entre los que al final sacaron la plaza ese porcentaje de acreditación de un perfil

al noventa y dos por ciento señorías desde luego algo falla cuando un colectivo que representa el treinta y seis por ciento a la hora de presentarse a una plaza por conocimiento del euskera y no conocimiento sino acreditación del perfil correspondiente luego se hace con el noventa y dos por ciento de los puestos desde luego yo creo que este dato

y de que las cosas no funcionan de forma justa en relación a respetar el principio de acceso en condiciones de igualdad en un puesto en la administración pública decía que todas estas situaciones

que legítimamente obviamente reúnen los requisitos y se presentan a una convocatoria pública viendo por ejemplo como el que tiene un pe ele dos que se puntúa dieciocho puntos pues al final les pasa en

de méritos y voy a poner otro ejemplo y según explicó el propio consejero la pasada legislatura en una comparecencia pública en una de las convocatorias

el conjunto de los aspirantes en la fase del examen es decir en la fase de oposición que aprobaron el examen el porcentaje fue del setenta por ciento desde luego

como es la situación se valora el pe ele dos con dieciocho puntos que equivale a todo el máximo que se puede acreditar en la formación todo el máximo que se puede acreditar en la formación eso son dieciocho puntos que es muy difícil que todo el mundo pueda acreditar

suficiencia investigadora grado de licenciatura curso de doctorado es decir aquí

pero a la hora de concurrir en este caso por ejemplo como médico a la administración ya puedes tener toda la formación que quieras que se te va a valorar como máximo dieciocho puntos igual que el pe ele dos dieciocho puntos

un doctorado se te va a valorar menos que ese pe ele dos que son dieciocho puntos y ese por ejemplo máster postgrado se te va a valorar siete puntos y medio eso de acuerdo a la resolución que aprueba las bases de la última convocatoria de la ope

por lo tanto viendo por ejemplo ese porcentaje de aprobados de un setenta por ciento en la fase de oposición

en un elemento determinante porque al final en igualdad de condiciones

en aprobar ese examen obviamente el que tuviera ese pe ele dos vemos que claramente pasaba a otros aspirantes que ya podían tener muy buena formación y muy buena experiencia pero desde luego muy difícil llegar a esos dieciocho puntos argi dago honek

gehiegizko balorazio hori berrikustea por lo tanto consideramos una vez más que el gobierno vasco tiene que rectificar su política

popular presentamos nuevamente hoy esta iniciativa para debate en esta cámara uste dugu esan dudanez ezinbestekoa dela politika

que ha llevado oposición tras oposición a que muchos ciudadanos

empleo en la administración pública luego tenemos las clásicas disfunciones que se producen y que exigen también una revisión del sistema

en cuanto también a la fotografía que tenemos final una vez celebrado un proceso de selección de personal en la administración pública

precisamente sirve para que las personas que acreditan ese conocimiento del euskera ese nivel obtengan los mejores puestos en la escala

destinos pero que casualidad luego nos vamos por ejemplo a la categoría de médicos y cuando se eligen los destinos

la demanda del euskera desde luego no tiene que ver con otras zonas de nuestra comunidad autónoma o cómo plazas perfiladas

centros de salud en distintas categorías profesionales están sin cubrir se produce esta anomalía que desde luego también

conveniente corregir y desde luego creemos que una mayor exigencia del euskera

aquí vemos y creo que es algo muy triste para los que nos consideramos euskaldunes tenemos el lujo de poder conocer y hablar esta lengua desde la absoluta libertad que la gente que los ciudadanos vascos

euskera para acreditar un perfil y luego ese título se guarde en el cajón desde luego

y si no no hay más que pasearse por muchas administraciones públicas

que en su día acreditó un determinado perfil desde luego hoy no tiene un nivel suficiente en euskera no domina suficientemente el euskera

que me parecen importantes dos acuerdos uno en el año dos mil nueve cuando

era lehendakari con los votos por cierto del partido popular y hablábamos de mostrar nuestra solidaridad con todos los trabajadores

este acuerdo también hablaba de realizar una valoración adecuada del euskera

ope hablábamos de que era necesario garantizar el principio de acceso en condiciones de igualdad a la función pública

de que se elaborara un informe por parte de osakidetza en relación a las distintas resoluciones de las ope cómo se habían adjudicado las plazas cómo se iban a

a las que yo hacía referencia esta vez hemos presentado una nueva iniciativa

señores del partido socialista que la iniciativa que hemos presentado es calcada a la iniciativa o al acuerdo al que llegamos el partido socialista upyd y el partido

los primeros párrafos hablan de modificar la normativa correspondiente a la asignación de los perfiles lingüísticos de cada puesto a revisar la puntuación del euskera en las futuras ope para adecuar ese conocimiento a la realidad sociolingüística de cada zona y cómo el parlamento vasco también

de acceso en condiciones de igualdad a los puestos de trabajo y a las sustituciones estos dos párrafos que ustedes firmaron

lo firmaron no sé si porque ya estaban en campaña electoral o estaban preparando ese famoso vídeo

en la campaña electoral y que planteaban claramente la modificación de la política lingüística son los mismos dos párrafos que hoy plantea el partido popular

que defender hoy esa posición contradictoria con la defendida en el mes de mayo y con

que vienen en su programa electoral que son además precisamente los que ustedes aprobaron en ese acuerdo que es hoy los

en esa iniciativa qué ha cambiado una cosa muy sencilla simplemente el partido socialista

un acuerdo que suscriben con el partido popular y upyd en mayo y que hoy se trae a esta cámara pues lo van a votar en contra

planteamos esta iniciativa tengo que decir que no estamos de acuerdo con la enmienda

a la política lingüística en esta comunidad autónoma con la exigencia de que todo el mundo pueda acreditar un nivel de euskera aunque sea el requisito mejor dicho indispensable para ocupar cualquier puesto en la administración

no favorece nada a la convivencia lingüística va en contra el sentido común de las cosas a la realidad sociolingüística y desde luego creemos ez diola mesederik egiten

el partido nacionalista vasco se mueve en esa indefinición pero al final lo que pretende es seguir como estamos

de la mano con el partido nacionalista vasco y los peajes de estar en un gobierno y tocar poder

hayan hecho una pirueta mejor dicho un triple salto mortal respecto a la posición defendida en esta cámara

lehenengo puntua el parlamento vasco insta al gobierno vasco a rectificar la política lingüística injusta

como requisito indispensable para optar al empleo público buelta emanda bigarrena

biak dira hizkuntza ofizialak koofizialak bigarrena el parlamento vasco insta al gobierno vasco a modificar los criterios de acceso a las ofertas de empleo

sobre la capacitación técnica y la experiencia zer pentsatuko zenukete guk proposamen hori aurkeztuko bagenu

y eso es tan sencillo como que cada hablante decida en qué idioma quiere comunicarse ni más ni menos

de usar el idioma en el que quiere comunicarse bai euskaraz ala bai

como tampoco ningún ciudadano puede imponer a otro en qué idioma debe comunicarse aquí no cabe aplicar obligatoriedad alguna

en el ámbito de las relaciones entre sujetos privados otra cosa es en la relación entre el sujeto privado y la administración pública los derechos lingüísticos

plural y abierta entendemos que es a las instituciones a las que compete el amparo y la salvaguarda de los derechos lingüísticos y la promoción del uso del euskera hablaba de conciliación de derechos al inicio de mi intervención una conciliación de derechos que debe ir acompañada de la máxima eficacia en el uso de recursos públicos pero también

de acceder a la función pública por eso creemos que es fundamental la adecuación de los perfiles lingüísticos a la cambiante realidad social y sociolingüística

de los que le hablaba al principio y para garantizar por otra parte que cualquier ciudadano o ciudadana pueda ser atendido en el idioma que elija acude a un servicio público pero para hacerlo de forma racional y solucionando las disfunciones que se hayan producido en la implantación de los diferentes perfiles exigidos si de hecho los ha habido por eso propusimos y proponemos algo tan sencillo como una revisión

sin juicios previos como algunos quisieron hacer creer con sinceridad proponiendo de alguna manera que se revisen de arriba abajo con calma como decía

rebajados o deben de ser revisados al alza simple y llanamente una revisión sincera objetiva para saber si esos perfiles se adecúan o no a las exigencias necesidades o prioridades al respecto del uso y de las exigencias de los ciudadanos

la pirueta que hemos hecho me ha pedido usted explicaciones bueno

como me ponía con mi madre cuando llegaba tarde a casa y le tenía que dar explicaciones

nuestra propuesta electoral y la propuesta que está incorporada al programa de gobierno otra cosa es que ustedes dentro de sus interpretaciones dentro de los fantasmas que les recorren ustedes hayan pensado que nosotros estábamos

las exigencias en cuanto a perfiles lingüísticos revisarlas no rebajarlas que es muy distinto habrá que rebajarlas si verdaderamente se observa

exigir el perfil de euskera pero tampoco vamos a tener ningún complejo en solicitar que se eleve el perfil de euskera cuando realmente se debe de elevar y ese perfil es absolutamente insuficiente atendiendo a la realidad sociolingüística o al puesto administrativo que está ocupando ese funcionario

con lo que se presentó en su momento con lo que llevábamos en nuestro programa de gobierno y con lo que hemos presentado hoy ni más ni menos

otra cosa es que usted quiera pensar que nosotros estábamos alineados con sus posicionamientos y no es así ustedes están diciendo que se elimine el requisito del euskera y nosotros le décimos que no nosotros estamos diciendo que hay que garantizar el uso del euskera que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país tienen derecho a dirigirse a la administración en el idioma que elijan todo el derecho a ser atendidos y lo estamos defendiendo y lo defenderemos hasta el final ahora creemos que hay puestos en la administración

no requieran perfil o que haya otros que tengan un contacto directo con los ciudadanos pero que quizá debieran tener una prioridad por ejemplo en la solvencia oral de esa persona o en la escrita

como eso en fin la señora ubera decía que teníamos que tomar muchos ejemplos del compañero ximo puig le voy a hacer una corrección antes de que el señor puig estuviera con

estuvo previamente con nuestra secretaria general idoia mendia que probablemente tuvo bastante más capacidad de convencerle por cuestión de cercanía ideológica

pero en cualquier caso también le voy a decir otra cosa en la comunidad valenciana por desgracia han sufrido una política lingüística que creo que nada tiene que ver con la que hemos tenido aquí porque la comunidad valenciana me reconocerá que durante muchísimos años el gobierno

ha ninguneado absolutamente al valenciano y le puedo asegurar que conozco muy muy bien la realidad de la comunidad valenciana y no la que está más pegada a las playas

la que está en el interior y conozco cuál es la realidad sociolingüística también le digo una cosa

a cualquier funcionario de la comunidad valenciana creo en fin quizá con cierta dificultad pero probablemente sin tener ni idea de valenciano probablemente

cosa que probablemente a la inversa no sucedería pero bueno ese es otro tema totalmente diferente pero ya le digo yo afortunadamente me alegro que reconozcan

haya puesto pie en pared con las políticas lingüísticas que estaba desarrollando anteriormente el gobierno del partido popular eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

teknologia berria erabiltzen vamos a demostrar

no lo hacen gracias al euskera sino a sus conocimientos profesionales experiencia cursos e idiomas entre los que se encuentra también el euskera

es garantía de protección de los derechos lingüísticos de los vascos y de las vascas

el euskera es una cuestión de calidad y de dignidad una administración

el euskera es mayor calidad para la ciudadanía y es un plus de calidad para el funcionario vasco para la empleada pública vasca porque significa respeto que es un valor de ida y vuelta respeto de la administración a su pueblo y del pueblo a su administración y sentido de pertenencia

es una señal de servicio público digno y bueno ciertamente es hora de tratar con respeto a toda la ciudadanía

consigue entrar en la administración es hora de dejar de utilizar el euskera como arma arrojadiza y ponerla en el lugar que le corresponde

una lengua que a pesar de su situación de igualdad legal como se ha dicho aquí con respecto al castellano necesita especial protección para garantizar su verdadera equiparación social y todo esto lo digo en castellano con acento vasco y a mucha honra ahora voy a hablar en euskera no con acento catalán que lo desconozco

con la entonación particular de cada lugar aldian aldian eta etenik gabe

zuek badakizue dekretuak zorrozki betetzen direla existen datos que pueden romper de una vez por todas la falsa dicotomía

entre buenos profesionales excluidos por su falta de conocimientos de euskera y malos profesionales que han conseguido su puesto gracias a esta lengua cómo se ha valorado en los méritos las últimas ope

dos se ha valorado entre un cinco y un siete coma cinco por ciento aunque la ley

el pe ele tres se ha valorado entre un diez y un once por ciento y se puede valorar hasta un veinte por ciento el pe ele cuatro se ha valorado entre el quince y el diecisiete por ciento y la ley dice que puede valorarse hasta un veinte por ciento

oposiciones para administrativos auxiliares y subalternos

no los ha concretado pues yo tengo aquí la ope del dos mil once en estos tres cuerpos en administrativos auxiliares y subalternos la

incluso en el cuerpo de subalternos y auxiliares se valora más la suma de títulos informática y otros idiomas más que el conocimiento del euskera

aun así hay una verdad que demuestran los datos en las oposiciones quienes obtienen los primeros puestos

mejores y estos hombres y mujeres los mejores funcionarios vascos son saben euskera y vamos a dar algunos ejemplos médicos de familia los últimos datos de que disponemos y que han podido cambiar en la resolución definitiva

de los cien primeros clasificados tras el examen escrito específico setenta y uno

ocho acreditaban un perfil inferior mientras que veintiuno no acreditaban ningún conocimiento

miremos al año dos mil ocho oposición del gobierno vasco a administrativo

treinta y seis la habrían conseguido aunque el euskera no se hubiera valorado de treinta y siete treinta y seis

en esa misma oposición vemos el grupo de auxiliares administrativos

en el noventa y siete por ciento de los casos no se producirían cambios en caso de que no se valorase el euskera

también ellos y ellas son las mejores y además saben euskera

no ha sido valorado pues bien de ciento cincuenta y cinco ocho casos se habría producido un cambio de titular por tanto en el noventa y cinco por ciento de los casos no habría habido cambio alguno por acreditación

tenía preparado un pequeño ejercicio en el que sustituía al inglés por el euskera

de la proposición pero ya ha hecho la señora ubera algo parecido

para que se pueda apreciar lo ridículo de la misma lo ridículo de la propuesta y lo fuera de lugar

los partidos debemos apostar porque derechos lingüísticos acceso a la función pública y convivencia en las dos lenguas sean los objetivos prioritarios

que vaya en consonancia no solo con la realidad sociolingüística sino que en el ámbito de las competencias comunicativas que se requieren para el desarrollo de las distintas actividades y funciones el objetivo es el de hacer que los usuarios de la administración se sientan

con una política de incentivos y con los medios necesarios para que fomenten su carrera profesional cómo no es decir hacen falta más medios

lo dijimos en el debate de presupuestos para mejorar en este ámbito y los responsables de que no haya más recursos destinados al euskera son los partidos que aprobaron los presupuestos en esta cámara

absolutamente nada para combatir esta falta de recursos

ni adelante ni atrás en lo que se refiere a la normalización del euskera y señora garrido decía usted bueno yo quería anotarle la realidad socio lingüística

no se puede presentar esa realidad aquí en un discurso como una foto fija y menos en lo que respecta al proceso de normalización del euskera y desde luego

dice usted que le parece mal que se valore más el euskera que otras formaciones

no le parece una formación exigente que se pida

o ega de cara a una carrera profesional es decir que se pida acreditar al menos una capacidad de bilingüe eso no es formación

el euskera y el aprendizaje del mismo sin duda alguna

seguro que el malestar de aquellos opositores de los que ha hablado usted tiene más que ver con el hecho de que no se convoquen suficientes plazas cosa

o con que los temarios que se presenten se presenten tarde y mal quizá el malestar de los opositores tiene más que ver con eso que

es un avance que la gente que muchos ciudadanos vayan a aprender euskera

para acreditar un título para presentarse a una oposición y que luego ese título se guarde en un cajón y como le ha pasado

se dirige a funcionarios que se supone que tienen el título de ega sacado hace no sé cuánto tiempo y ahora no son capaces llevar una conversación en euskera eso es ser equilibrado eso es fomentar el euskera es decir por exigir mayores perfiles lingüísticos en la administración estamos realmente ayudando al euskera a fomentar su uso

personal yo ayer fui a recoger a hacienda las pegatinas de las etiquetas para hacer la declaración de la renta había una serie de puestos

y en una se atendía en euskera eta ipintzen zen argi eta garbi nik euskaraz erabiltzen dut

pero obviamente como estábamos en una fila paralela al mostrador pues se

se oía exactamente las conversaciones se podía distinguir prácticamente o sea se distinguía perfectamente el idioma

que me dirigí yo en euskara a la administración en la hacienda

seguramente a lo largo de la mañana serían más personas pero se estaba garantizando el que yo me hubiera podido dirigir en castellano pero elegí dirigirme en euskera

pero eso no significaba que todos los funcionarios que estaban en todas las ventanillas en álava tuvieran que saber euskera seguramente si estuviéramos en gipuzkoa

que el sistema funciona bien cuando he citado el ejemplo me decía

cuatrocientos diecinueve puestos en la administración de todos los aspirantes que se presentan el treinta y seis por ciento acredita el nivel de euskera

en esa convocatoria los que acreditan el nivel de euskera son el noventa y dos por ciento dígame usted a mí o los que ya saben euskera son el noventa y dos por ciento dígame

porcentaje de esa forma tan desproporcionada dígame si con este dato este dato no significa que el euskera no es determinante a la hora de acceder

y como se exige en relación a otros méritos me decía

me hacía por hacer una referencia al partido socialista y voy acabando señora presidenta

su participación en el gobierno desde luego el video que sacaron en la campaña no se lo puso encima de la mesa ese video

desde luego ese video que hicieron a lo largo de la campaña y que con el que nos deleitaron a lo largo de la campaña no y por acabar con el señor andueza yo no sé por qué no vota hoy a favor de la propuesta del partido popular

pero si es idéntica a la que ustedes aprobaron con nosotros el veintiséis de mayo de hace un año pero si es la misma si además lo que he hecho deliberadamente es traer

el partido popular sistemáticamente todas las legislaturas porque la política lingüística no cambia

una revisión de las exigencias del euskera que el idioma no puede ser un elemento de discriminación en el acceso a la administración garantizar que libertad e igualdad vayan de la mano todas esas cosas son las que decía idoia mendia

y ustedes tendrán que por qué explicar son ustedes y si no
voten la propuesta del partido popular que es la que ustedes votaron en el mes de mayo del año pasado eskerrik asko

nosotros estuvimos en el acuerdo del ochenta y dos y desde entonces

todos los grandes avances que se han dado en esta cuestión han tenido también con protagonismo a los socialistas

una vez de que ustedes hayan entrado en el ámbito de la política participen también como nosotros hemos participado desde hace más de treinta años en esta cuestión de momento le voy a decir que en casi medio año que llevamos de legislatura no se han empeñado mucho en prestarle atención a esta cuestión porque creo que iniciativas al respecto han presentado muy poquitas

que no solo por convicción sino en su día a día demuestra preocupación y nos pone propuestas encima de la mesa que tendrán mayor eco mayor éxito o mayor o menor acuerdo pero lo hace por tanto le invito a que

iniciativas nosotros como partido internacionalista tenemos muy pocos complejos con estas cuestiones por tanto siempre estaremos dispuestos a trabajar en beneficio de cualquier

minoritaria o menos minoritaria por tanto si el ánimo verdadero es el de trabajar en beneficio del euskera euskararen alde egitea bada helburu

yo creo que en fin que el haber hecho la comparación señora ubera del

cualquier ciudadano o ciudadana vasca a entrar a trabajar en la administración con participar en la behobia más que una frivolidad me parece de una majadería absoluta

bastante más nivel bastante más capacidad y bastantes más argumentos como para venirnos con eso

de eso venga aquí y pónganos ejemplos más serios que ese porque eso primero ni se ajusta a la realidad y le digo que no está a su nivel político que me ha parecido una majadería se lo digo

en esto también en esto también señora garrido

trae a esta cámara competiciones de amor de este tipo porque esta ha sido una competición de golpes vale pues usted está enamorada del euskera

bienvenida eskerrik asko ongi etorri oso ondo primeran bikain ederto pero no venga a frivolizar con estos temas

que ya le digo que no y si usted quiere pensar que lo que firmamos en su momento es lo que usted nos ha argumentado aquí le vuelvo a repetir que está muy equivocada

que no si usted está de acuerdo con nosotros en que hace falta revisar los perfiles del euskera cosa

estos señores nosotros el gobierno que está en el acuerdo súmense no pasa nada si nosotros tenemos una gran diferencia con respecto a ustedes mire que tenemos una diferencia

que nosotros sabemos evolucionar y además tenemos capacidad para evolucionar

está perfectamente pasado ya y que de aquello había que pasar a los hechos y los hechos eran en fin que sin ningún tipo de complejo y sin realizar ningún

de juicio previo se pueden revisar los perfiles y le he dicho antes y se lo volveré a repetir y era lo que quería decir el vídeo aquel de campaña que usted raca raca raca nos trae aquí que lo único que pedíamos es que se revisaran

no para eliminar perfiles primero para garantizar el uso del euskera

el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas vascas a ser atendidos en euskera segundo para garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad autónoma

ajustarlos por qué porque en algunos casos el perfil que se exige puede ser desproporcionado ojo y en otros no y en otros igual es escaso igual tenemos que exigir más perfil y no vamos a tener ningún complejo pero yo estoy convencido que si traemos una casuística como la última que le acabo de mencionar probablemente ustedes digan no

sí por tanto en fin yo le invito a que al igual que hacemos continuamente los socialistas

pero bueno usted insiste en venir aquí e incluso de una manera un poquito irrespetuosa

autoalimentar su discurso que es identitario y excluyente ese es el objetivo de esta iniciativa

durante muchísimos años nuestro compromiso en este caso y con esta cuestión es la de venir y tratar de ser útiles para la ciudadanía y tratar de cumplir con las demandas que los colectivos exigen en este caso nuestro compromiso se resume en colaborar y trabajar para que se vea cumplido ese derecho que

exigen de ser atendidos en lo que es su idioma

pero con la administración pública un derecho que tiene que estar garantizado y que en este momento no está garantizado un servicio que no está garantizado y como idioma oficial que es tenemos que garantizar por lo tanto por favor no

este debate aquí un debate que es artificial un debate que por mucho que usted insista en que es la realidad no lo es es un debate que vosotros intentáis imponer ante la realidad colocándoos muy al margen del tablero de la sociedad vasca y

ni el tiempo de todos ni los recursos de la ciudadanía en mantener debates artificiales de este tipo

no me he referido a su partido en ningún momento entiendo que se ha dado por aludido por alguna

aun así me alegra que preste atención al trabajo que nosotros estamos haciendo

del euskera y de esta cuestión no es nuestro objetivo obtener titulares sino ser útiles y a veces las iniciativas no tienen tanto calado como ha dicho no tienen tanto recorrido pero desde luego nuestro compromiso nuestra convicción al servicio de la sociedad civil al servicio de las demandas que estas personas y que estos colectivos hacen al respecto de lo que supone la normalización del euskera de los recursos que requiere

y eso es a lo que hemos venido aquí eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna eztabaida amaitu denez

alderdi sozialistaren erantzuna sí desde el primer día dijimos que estábamos en desacuerdo

que se venían realizando en euskadi con plena satisfacción en cuarto de primaria y en segundo de eso por las evaluaciones

no entendemos y la mayoría de la comunidad educativa en euskadi un sistema de diagnóstico que estaba funcionando muy bien para aplicar

pese a proclamarse que se está en desacuerdo con ella donde dije digo digo diego hirukote polita eaj

zer adostu duzuen eta puntuetariko bat da participación del país vasco en dotaciones del fondo social europeo para el desarrollo para la ley de educación

serán cofinanciadas por dicho fondo que cofinanciará los costes al cincuenta por ciento

gracias presidenta en la proposición no de ley que debatimos hoy aquí a propuesta de eh bildu sinceramente no sé si calificarla

casualidad cuando menos es curioso que justo coincide esta iniciativa hoy con las huelgas de educación convocadas por los sindicatos que se produjeron el martes dieciséis y la que está convocada para el próximo martes día veintitrés porque

y también el currículum vasco exactamente lo mismo que hoy piden ustedes con esta iniciativa y yo solamente quiero decirle señora ubera que colgarse medallitas

lo difícil es transitar el camino necesario hasta lograr la aspiración de conseguir una verdadera ley de educación vasca en este país

no quiero con esto quitarle la razón a su propuesta

a que tengamos que hablar cuando usted quiera de lo que usted quiera y en los términos en los que usted quiera plantearlo porque eso no es la forma de transitar este camino nosotros sabe usted perfectamente que estamos absolutamente en contra de la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa

calidad la diferencia es que mientras que algunos de ustedes hace unas cuantas décadas estaban en otras cosas nosotros nos estábamos dedicando a implantar las bases de una educación pública y de calidad de la misma forma que lo hicimos en su momento

vamos a seguir trabajando en ello por lo tanto a nosotros no nos puede dar usted lecciones en ningún caso de defensa de la educación pública ni en este país ni en el conjunto

nos da la sensación de que la escuela pública vasca como tal y estoy hablando no de eso que se llama escuela vasca en general sino de la escuela pública vasca

paulatinamente en este país yo oigo en declaraciones públicas muchas veces hablar de la escuela vasca pero muy pocas veces hablar de la escuela pública vasca y creo que eso es algo que no podemos permitirnos porque está habiendo es evidente y yo no voy a entrar en la guerra de cifras sobre si ha habido más

pero es evidente que existe un descontento especialmente en la red pública y que no podemos retroceder en educación lo que con tantos años de trabajo se ha conseguido a lo largo del tiempo en este ámbito y ese sigue siendo hoy en día

la cartera de educación un empeño de los socialistas por eso proponemos un pacto educativo que sé que usted comparte que termine configurándose en una nueva ley vasca de educación con el consenso amplio de todos los agentes educativos que forman parte en esta tarea

y todas las especificidades que tiene la educación vasca teniendo en cuenta que existen ahora nuevas demandas y necesidades de una sociedad que como todas está en constante cambio porque todos sabemos que tenemos un sistema educativo muy específico en este país que respetamos

en que la escuela pública ha de ser el referente del sistema y como dice la actual legislación el resto la privada la concertada debe ser subsidiaria de la escuela pública porque estamos hablando desde la administración eso hemos venido manteniendo a lo largo de los tiempos hemos trabajado en una línea de continuidad en la que pensamos que hay que seguir

con eso que se viene a llamar el currículum vasco y que las seguimos manteniendo en este momento y el que compartamos el mismo gobierno no quiere decir que comparta y esté de acuerdo con todas y cada una de las políticas que pone en marcha cada uno de los departamentos y aquí la consejera sabe perfectamente porque no lo hemos escondido que tenemos desacuerdos en el tema de heziberri como los tenemos públicamente también en el tema de la lomce pero no estamos dispuestos a venir aquí a enredarnos dando vueltas en el mismo círculo

es avanzar y mejorar porque hay muchísimo trayecto por recorrer porque mientras nosotras y nosotros estamos parados entretenidos en estas discusiones muy amenas los demás avanzan y europa todavía más y la distancia que mantenemos con ellos se va haciendo cada día mayor

tampoco creemos que haya que desarrollar aquellos elementos que no sean preceptivos

la calidad de nuestro sistema porque lo que conseguiremos sino es dificultar los años académicos realizados por alumnos y alumnas y ponerles al final

cuando nosotros no estamos aquí para eso sino para intentar ofrecer una educación de calidad porque supongo que todos coincidiremos y tendremos amplio consenso en que el futuro de euskadi se juega en las aulas de verdad en las aulas de este país por ello nuestra propuesta es poner a la cabeza del sistema educativo la educación pública mediante un gran pacto educativo con el objetivo de estructurar reforzar la estabilidad y la calidad de la educación vasca avanzando hacia la excelencia

creo que debiéramos encontrar un suelo que yo creo que existe un gran suelo común para poner en marcha ese gran pacto educativo que esperamos que se haga con el mayor consenso posible

especialmente en educación es la única forma de hacer educación de verdad

troncal y necesario para el desarrollo de un país porque sabemos que la educación debe ser entendida como una inversión de futuro que esta sí de verdad genera

y en competitividad pero hay que hacerlo también con garantías y yo no dudo del compromiso de todos ustedes ni con la educación ni con la necesidad de este pacto educativo

en esta discusión yo entiendo que a ustedes les apetezca políticamente sacarle brillo a las movilizaciones

tanto mejor pero no me parece que eso sea lo más importante ni el problema fundamental que tenemos en este país sino atender esa demanda que existe lo reconozco

intentar ponerlo remedio por ello instamos al gobierno vasco a que desarrolle un sistema de evaluación que permite de verdad verificar la grado de adquisición de las competencias básicas

con el fin de disponer un mecanismo fiable riguroso y continuo

del sistema educativo de nuestra comunidad pero contando con todos los partidos políticos de esta cámara y con todos los agentes educativos para alcanzar el consenso necesario

es bastante complicado porque para analizar la salida del sistema

teniendo en cuenta todos los perfiles del estudiante pero tenemos que avanzar desde nuestra propia

creemos que es pensar en la calidad de nuestro sistema teniendo como eje ya sé que soy machacón pero creo que debo repetirlo porque se olvida muchas veces en los discursos públicos y oficiales

para alcanzar la excelencia y ser competitivos para ello

la única solución la solución que de verdad da respuesta a los problemas que tiene la educación es caminar hacia una nueva ley vasca de educación

bueno vamos a ver cuando recibimos esta propuesta de

es que ustedes aquí lo que dicen es quitar quitar quitar quitar y no nos presentan nada en lo que podamos acordar

y el grupo nacionalista vasco y no nos hemos podido unir a ella porque es que verdaderamente no habla de lo que estamos tratando de lo que trae aquí el grupo

por eso no nos hemos podido unir a ella pero ya analizando lo que nos trae eh bildu aquí lo que nosotros vemos es que la concepción de la educación que presenta este grupo es muy muy opuesta a la que tenemos nosotros para empezar describe el modelo como absolutamente punitivo y calificativo

la excelencia que yo creo que todos perseguimos necesita

validada necesita ser validada aquí no se nos presenta un mundo donde nadie puede ser castigado y por tanto nadie puede ser premiado y les voy a decir algo la posibilidad de que se valide la excelencia de un alumno se hace

puede demostrar su capacidad de esfuerzo además de cualidades propias que tenga pero sobre todo su capacidad de esfuerzo el modelo que se nos presenta aquí es un modelo donde el esfuerzo no sirve para nada no sirve para nada porque se no se valida y como no se validad pues

entonces nos parece especialmente grave por una razón porque siempre hemos dicho yo creo que todos seguiremos estando de acuerdo que la educación entre otras finalidades tiene la finalidad de la movilidad social

son unas terminologías del siglo veinte que a mí todavía

me cuesta entender que hoy en día se sigan usando pero una de las finalidades de la educación y de la validación de la excelencia es

o la hija y voy a utilizar su terminología de un hombre

a seguir los pasos de sus progenitores y garantizar que el hijo o la hija de unos padres ricos

que vaya a disfrutar de los mismos privilegios la movilidad social que es algo que creo que tenemos todos que buscar aparte de por ganar la loto que lo cual es

yo lo sigo intentando pero aparte de por ganar la loto se da por validar la excelencia por dar oportunidades a la excelencia

nos presentan aquí dice que cualquier validación es punitiva perdón cualquier validación es

sobre todo gratificante para la excelencia porque se puede demostrar eso por una parte

eso no quiere decir que a la persona al alumno alumna que no obtenga unos resultados no haya que prestarle

un apoyo especial y exigirle un esfuerzo porque miren yo no sé si es que ustedes aquí hay mucha gente muy joven que no ha vivido la vida pero la vida es fundamentalmente esfuerzo y uno de los sitios donde nos entrenamos

es en las etapas educativas no esfuerzos desmedidos no esfuerzos que hagan a nadie perecer bajo el peso pero sí

y mejor favor que podemos hacer a nuestras hijas e hijos es entrenar ese músculo ya para ir a lo concreto

que no les llega lo que ustedes dicen de la lomce

no aplica porque el decreto ley cinco barra dos mil dieciséis de medidas urgentes para la implantación de la ley orgánica

tiene el siguiente contenido y es que se lo cito

porque es que se lo ha dicho todo el mundo y no parece que lo absorben de este modo hasta la entrada en vigor de la normativa del pacto de estado social y político por la educación

consistirá en una prueba sin efectos académicos

porque además ni tan siquiera se va a realizar a todo el mundo va a ser un muestreo va a ser un muestreo abro comillas y de carácter muestral como les acabo de explicar mientras que en el caso del bachillerato se realizará una prueba de características semejantes a la hasta ahora vigente de la prueba de acceso a la universidad

a los solos efectos de acceso a la universidad además durante este periodo el objeto de las pruebas se limitará a las materias troncales del último curso de cada etapa educativa cierro comillas o sea que yo creo que ya queda claro que

no están en vigor respecto a las evaluaciones que yo creo que se han hecho

ha estado haciendo valoraciones de evaluaciones de cómo va es que son absolutamente necesarias son absolutamente necesarias porque en vez de ser punitivas y angustiosas y pobres niños y pobre profes son una herramienta de mejora

si vamos bien o vamos mal y no se trata de castigar a nadie se trata de utilizarlo como una herramienta y por eso nosotros lo vamos a apoyar en resumen primero las evaluaciones son una herramienta para validar la excelencia y el esfuerzo y por tanto para facilitar la movilidad social que esa persona que tiene unos niveles

unos niveles de excelencia tengan vías abiertas para

toda la ayuda que se le pueda dar etcétera etcétera es decir son una herramienta de movilidad social y por tanto una herramienta de futuro para euskadi en este caso por otra parte

y respecto de heziberri con el que nosotros no estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo primero porque consideramos que tiene

apartados es que valoramos las capacidades en doce me parece que es me disculpo si no soy exacta pero creo que son doce capacidades nos parece

es formación porque es muy distinto enseñar

que enseñar que adiestrar en la capacidad para llegar por uno mismo a esos contenidos

estamos aplicando capacidades es decir la capacidad

no los contenidos mismos pues creemos que el profesorado necesita una formación que hasta ahora no tiene pero sin embargo tanto a nivel de toda españa como a nivel de euskadi hay dos cosas pendientes que son el pacto

en los dos niveles y nosotros esperaremos a ese pacto por la educación para plantear las cosas con las que no estamos conformes y desde luego el gobierno y los grupos que lo apoyan nos van a tener ahí para colaborar y cooperar porque llegamos al pacto con verdaderamente

pero ya les digo nosotros las evaluaciones creemos que son una puerta no para castigar sino para premiar para premiar y por tanto que tienen efectos positivos para premiar y para ayudar

y por tanto el camino de la movilidad social y el camino de la mejora para todo euskadi muchas gracias eskerrik asko bengoechea

mahaiburu andrea legebiltzarkideok bueno debatir hoy sobra la reválida nos permite profundizar en lo que realmente

hemos pronunciado y o escuchado en la calle alguna vez no a las revalidas comencemos esta intervención situando el tema

qué suponen para el sistema educativo qué relación tienen con heziberri dos mil veinte y cuál es la situación actual de las mismas

de constantes cambios improvisaciones a golpe de decreto un proceso mal informado y sin debate previo y que ha generado

un proceso que también ha influido en euskadi y en el diseño de heziberri dos mil veinte en primer lugar miremos a madrid tenemos la lomce es decir la ley orgánica ocho barra dos mil trece del nueve de diciembre

una ley aprobada por una mayoría absoluta del pp y rechazada por la inmensa mayoría de la comunidad educativa una ley a golpe de boletín de arriba abajo que a día de hoy como veremos a continuación está siendo desmantelada por sus propios promotores

el ministerio de educación cultura y deporte aprueba el veintinueve de julio de dos mil dieciséis no por casualidad

el real decreto trescientos diez barra dos mil dieciséis por el que se regulan las evaluaciones finales de educación secundaria obligatoria y de bachillerato las conocidas como reválidas esto es son dos evaluaciones a modo de examen

de obligado cumplimiento de carácter sumatorio y que tienen efectos administrativos esto es dos evaluaciones necesarias de aprobar

es decir en el caso de la reválida de cuarto de la eso nos encontramos con un alumnado que tras trece años de evaluaciones tres años de infantil seis de primaria y cuatro de la eso

y centenares de exámenes parciales por decisión del gobierno les toca hacer otra evaluación y o examen más y en el caso de la reválida de bachillerato tras ciento veinte materias trescientos sesenta evaluaciones trimestrales y centenares de exámenes parciales se decide hacer otra evaluación final para poder así obtener el título

para supuestamente mejorar su calidad educativa es necesaria tanta evaluación tanto examen para mejorar la calidad educativa del alumnado no sería más eficaz

por qué quién sabe se trastoca la normativa en el tercer trimestre lo que supone un tercer cambio legislativo en un mismo curso

parece ficción pero no es real el caso es que se anuncia que estas evaluaciones se realizarán pero que no tendrán efectos académicos solo diagnósticos literalmente se informa que la evaluación final de educación secundaria obligatoria correspondiente a la convocatoria que se realice en el año dos mil diecisiete no tendrá efectos académicos

en cuenta para el acceso a la universidad pero su superación no será necesaria para obtener el título de bachiller pero ojo esta decisión será firme hasta que se llegue a un pacto por la educación porque es importante decir

para alcanzar el denominado gran pacto de educación social y político por la educación en resumen a día de hoy y fruto de la lomce nos encontramos ante un sistema educativo que somete

superando materias evaluaciones trimestrales exámenes parciales

evaluaciones externas un poco excesivo miremos ahora euskadi heziberri dos mil veinte el plan que pone en marcha el departamento de educación

un plan formado por tres proyectos un primer proyecto para la elaboración del marco de modelo educativo pedagógico un segundo proyecto en el que se diseñan los decretos curriculares de la comunidad autónoma del país vasco de educación infantil educación básica y bachillerato

ahora bien cuáles son las características del modelo de evaluación propio que propone el modelo educativo pedagógico del plan heziberri dos mil veinte curiosamente

muy brevemente heziberri dos mil veinte propone evaluar al alumnado por competencias y contempla utilizar evaluaciones diagnósticas evaluaciones formativas y evaluaciones finales

realizar una evaluación diagnóstica en mitad de la etapa en tercero de educación primaria de carácter opcional y cuyo diseño y corrección queda en manos del propio centro otra evaluación diagnóstica en sexto de educación primaria al final de la etapa que llevará a cabo el departamento de educación a través del instituto vasco de evaluación e investigación educativa isei ivei

otra evaluación final en segundo de bachillerato que es para la selectividad en definitiva un conjunto que en realidad son realmente todas necesarias dicho todo esto desde elkarrekin podemos queremos dejar bien claro que una cosa son las reválidas y otra las evaluaciones estamos en contra de las reválidas y somos parte de quienes una y otra vez

no a las reválidas pero ello no significa que nos opongamos a que el alumnado sea evaluado

hay que tener claro las siguientes cuestiones por qué hay que evaluar cómo cuándo y qué se tiene que evaluar quién debe participar en el proceso de evaluación para qué evaluar desde elkarrekin podemos consideramos que sí hay que evaluar pero con criterio orden y sentido común

es una condición necesaria para mejorar la enseñanza las evaluaciones son parte del proceso de aprendizaje una parte muy importante de la evaluación

y cómo se enseña como el qué y el cómo se aprende dicho de otra manera dime qué metodologías de enseñanza y aprendizaje empleas y te diré cómo evaluar desde elkarrekin podemos consideramos que el afán que caracteriza las políticas neoliberales de cuantificar comparar de cara a facilitar la construcción de rankings

por ello desde elkarrekin podemos consideramos que los sistemas de evaluación necesitan revisarse proponemos una evaluación del sistema en su conjunto

solo es una parte del sistema apostamos por tanto por el diseño de una evaluación integral para el sistema en su conjunto y para los centros escolares

tienen que ser dinámicas y concebirse como un proceso de aprendizaje deben emplearse distintas formas de evaluar adaptadas a las necesidades del alumnado

y sobre todo deben diseñarse junto a la comunidad educativa

educación vasca con quién se ha contado para diseñar el sistema de evaluación según el modelo educativo pedagógico del plan heziberri dos mil veinte

un proceso que no ha contado con la participación de la comunidad educativa

no a las reválidas no a evaluaciones que en ningún momento tienen el objetivo de diagnosticar y no a un planteamiento de la educación como una carrera constante de obstáculos

que el modelo de las reválidas no está el servicio de la mejora de la educación que debería ser el objetivo básico está mucho más orientada a seleccionar segregar y sancionar que identificar los problemas y establecer medidas de mejora

sí a un sistema de evaluación integral y consensuado sí a evaluaciones que ayuden al proceso de aprendizaje sí a un modelo de evaluación que esté dotado de recursos y sí a una evaluación de competencias trianuales dentro de un plan general de evaluación del sistema educativo pensemos qué sistema educativo queremos y a partir de ahí valoramos qué tipo de sistema de evaluación se necesita no se puede caminar hacia metodologías de enseñanza y aprendizaje innovadoras y adaptadas a la realidad del siglo veintiuno y continuar utilizando herramientas de evaluación

la evaluación como parte de un todo como una herramienta de mejora el aprendizaje de conocimiento porque cuando la evaluación deja de ser un obstáculo de salvar

en una oportunidad para aprender mila esker eskerrik asko macazaga andrea

implantación de la lomce serán cofinanciadas por dicho fondo que cofinanciará los costes al cincuenta por ciento

sí mire señora ubera no le moleste a usted que hagamos valoraciones si valoramos o no la oportunidad de presentarlo o lo calificamos de oportunista tenemos nuestro propio criterio a la hora de establecer valoraciones sobre actuaciones de otro

a mí me interesa saber lo que piensa usted y me parece que es bueno que aporte usted sus propuestas sus ideas y sus valoraciones sobre lo que pasa y probablemente esa puede ser una diferencia entre cómo abordamos la actuación política ustedes y nosotros

lo que piensen los demás partidos políticos de esta cámara y me interesa sobre todo en un tema como este que seamos capaces de ponernos de acuerdo y nosotros vamos a tener que hacer también un ejercicio de diálogo también en el seno del gobierno vasco no todo lo que hace la consejería de educación es del gusto del partido socialista y probablemente para afrontar ese debate sobre la nueva ley vasca de educación

que se plasme con el mayor consenso posible en esta cámara con ustedes con elkarrekin podemos con el partido popular y con el partido nacionalista vasco porque me gustaría a mí que por una vez

de la discusión política y de tener que ir renovando los pactos educativos en función del color político del partido que esté en ese momento en el gobierno como pasa

como referencia por lo tanto le tomo la palabra y comparto su voluntad de intentar llegar a ese acuerdo y me quedo con ello y espero que a lo largo de los próximos meses podamos empezar

los que estamos en esta cámara y un amplio sector de la comunidad educativa que tiene mucho que decir también sobre lo que hay que hacer en este país eskerrik asko pastor jauna

propio de evaluación y por eso se está haciendo ahora el pilotaje y en radio euskadi la consejera de educación expresamente nosotros llevamos a cabo el pilotaje de las evaluaciones que nos den respuesta al perfil de salida de cada etapa con nuestro modelo planteamos qué competencias tiene que tener el alumno al final de cada etapa y queremos un diagnóstico

estamos haciendo un pilotaje queremos diseñar qué tipos de materias preguntas contenidos tiempos

en este curso estamos preparando este diagnóstico para decidir cuál es nuestro propio sistema de evaluación todos los agentes educativos y todos los que quieran van a tener su parte de participación

es que nosotros nunca calificaríamos ni lo hemos hecho nunca una

proposición del tipo que sea de ustedes de oportuna o inoportuna o fuera de lugar

a ver no estamos de acuerdo y lo manifestaremos no con el lenguaje que ustedes suelen manifestar su desacuerdo con nosotros que bueno está pleno de insultos calificativos denigrantes etcétera

pero se entenderá que es por el devenir de los hechos

pero siempre les tomaremos en cuenta y hablaremos

mire nosotros nos seguimos ratificando en la necesidad de evaluaciones por una razón todos sabemos que

todos hablábamos de igualdad pero ahora empezamos a hablar como una forma bastante más correcta de

equidad las evaluaciones ayudan a la equidad las no evaluaciones puede ser que igualen a todo el mundo pero no permiten dar

unos estímulos especiales ni a la persona que tiene más necesidades permiten ponerle apoyos especiales si queremos ser equitativos tendremos que conocer las necesidades de cada uno señora macazaga no sé si está por aquí

es que le voy a decir una cosa si nosotros estamos de acuerdo prácticamente con todo lo que usted ha dicho y puede contar con nosotros cara

al pacto usted ha hecho un desiderátum y quién no va a estar de acuerdo con un desiderátum intentemos convertir ese desiderátum en una realidad

lo único es que usted está diciendo estoy a favor de las evaluaciones pero en contra de las reválidas

que inventó o puso en práctica en circulación

y siguió hasta hace poco pero es que hoy en día no creo que haya en los documentos oficiales

una referencia a reválida no sí a validar sí a diagnóstico y sí

está hablando de reválidas y luego es cierto

que nuestros educandos tienen que pasar multitud de exámenes y pruebas puede ser que sean excesivos eso también podemos trabajarlo pero estas de las que hablamos tienen no sé si una ventaja pero

la panorámica general y ya le digo nos va a hacer mucho más equitativos y nos va a evitar tratar a todo el mundo igual no dando lo suficiente a los que no llegan y no proporcionando estímulos extras a los que se aburren porque superan ese nivel

solo hay una última cosa que voy a decir señor ubera pero para que vea que me tomo en serio me ha preocupado mucho cuando usted ha hablado

mire nosotros aquí aprobamos las cosas solidariamente y cuántas veces porque nosotros no hemos votado a favor salgo yo diciendo dios mío lo que hemos aprobado porque aunque yo vote en contra solidariamente si este parlamento vota a favor

aprobado entonces que una persona que pertenece a este parlamento hable de hacer plantes me preocupa porque

y consigue convencernos a todos y conseguimos llegar a un acuerdo sobre sus bases

lo van a respetar la legitimidad de verdad la da la aceptación de la aprobación solidaria

y ahora siendo parlamentaria es que las he aprobado yo
aunque haya votado en contra muchas gracias eskerrik asko bengoechea

nosotros creemos que lo que ha habido es sobre todo confusión falta de información a las familias

entregar resultados creemos que la información debería darse en comisión y no

y en relación a las reválidas nosotros vamos a seguir diciendo no a las reválidas y sí a evaluar pero evaluar un sistema educativo vasco y no solamente al alumnado porque también

que no hemos hablado de ellos pero supone una presión sobre los niños y niñas para que tengan resultados acordados a las pruebas estrés de control continuo y permanente

olvidando la curiosidad y la pasión por el conocimiento la selección de aquellos clientes que son buenos

tienen más dificultades de aprendizaje y son los que realmente más nos necesitan

de la función docente y la desconfianza hacia el profesorado ya que no es el profesorado quien tiene docencia directa con el alumnado el que evalúa pues se les expulsa del proceso de valoración final

degradación de contenidos se acaban estudiando lo que se examina y se centra el tiempo y los esfuerzos docentes en preparar al alumnado para resolver pruebas y exámenes

el control sobre el trabajo docente y la pérdida de la innovación educativa

sufriendo así un control directo sobre su trabajo y sobre lo que debe de enseñar y la publicidad de estas pruebas convierte la evaluación en un mecanismo entre centros y no de cooperación sí a la evaluación pero de todo el sistema integral no solo al alumnado y señora bengoechea me alegra que esté de acuerdo conmigo y donde digo diego